horiek onartzea en nombre del gobierno vasco comparezco para presentarles el proyecto de ley de presupuestos generales de euskadi para el ejercicio dos mil diecisiete

oro har inbertsio publiko handiagoa eginez batez ere berrikuntzaren alorrean directamente y sin dilaciones diré que a los

su compromiso con el modelo vasco de protección social conformado por los servicios y las prestaciones públicas esenciales en especial en el ámbito de la salud

y el empleo a través de una mayor inversión pública en general y en particular en innovación

ante la comisión de hacienda y presupuestos hace unas semanas se trata de un proyecto presupuestario que se ha elaborado en una coyuntura en la que la económica vasca ha alcanzado un importante ritmo de crecimiento

pero que al cesar estos está llamada a experimentar una cierta ralentización por más que las tasas de avance del producto interior bruto

estimables es más ahora se percibe que la fuerza de la inercia del crecimiento puede suponer un cierto sesgo al alza aunque también es cierto

ligada a procesos electorales y políticos que han tenido y tendrán lugar en nuestro entorno me gustaría situar el proyecto de ley de presupuestos generales para el presente ejercicio en su contexto económico para más adelante comentar también

del presupuesto de gastos por políticas públicas concretas y acabar haciendo una valoración

de los apoyos recabados y encontrados con los distintos grupos parlamentarios estos presupuestos para el ejercicio dos mil diecisiete se han elaborado en un contexto económico global de crecimiento moderado en el que las instituciones

de un modelo de crecimiento de china la salida de gran bretaña de la unión europea cuya negociación se inició

los procesos electorales en diversos países europeos y las consecuencias del previsible impulso proteccionista en los estados unidos donde por otra parte se ha iniciado ya una subida de los tipos de interés el año dos mil dieciséis la actividad económica mundial creció del orden del tres coma uno estados unidos limitó su crecimiento al uno coma seis

en uno coma nueve por su parte el buen resultado economías emergentes se debió por un lado al mantenimiento del impulso de china que creció un seis coma siete e india por encima del siete por ciento lado también a la menor caída que se produjo en relación al año dos mil quince

condicionados por el desplome de los precios de las materias primas

un tres coma uno por ciento una tasa que mejora en dos décimas el crecimiento alcanzado el año dos mil quince es el ritmo de variación más alto desde el año dos mil siete

que se tuvo el año dos mil ocho antes del inicio de la crisis reciente se trata de un modelo de crecimiento equilibrado desde el punto de vista sectorial ya que la industria y los servicios comparten protagonismo ambos con tasas de variación del tres por ciento

también es equilibrado desde el punto de vista del sector exterior a pesar de que la demanda interna es la que impulsa el crecimiento en cuanto al crecimiento de la economía mundial

lo cifra en un tres coma cuatro por ciento en lo relativo a euskadi las previsiones del departamento de hacienda y economía contemplaban cuando se presentó el presupuesto

del dos coma tres por ciento ocho décimas inferior al de dos mil dieciséis ahora bien la semana pasada tras constatar

precios hemos procedido a revisar al alza en dos décimas hasta el dos coma cinco

y hemos cifrado en un dos coma dos el crecimiento para el año dos mil dieciocho el crecimiento de la economía sería por lo tanto similar al que el banco de españa o el ministerio de economía dan para la economía española que también está cifrado

el empleo neto aumentó el año dos mil dieciséis en un uno coma nueve por ciento

dos mil quince y estimamos que ese empleo crezca en uno coma siete el año dos mil diecisiete y lo haga en uno coma cuatro el año dieciocho estos datos supondrán una creación de quince mil empleos este año

el año que viene no obstante a pesar de este alto crecimiento del empleo y de la generación

empleos desde el año dos mil catorce todavía hoy contamos con un diez por ciento menos de empleo que antes de la crisis y con una tasa de paro del doce coma tres por ciento una tasa de desempleo que se estima que llegué al doce coma uno como media el año dos mil diecisiete y al once coma siete también en términos medios el año dos mil dieciocho hay mucho camino que recorrer para la recuperación de la ocupación perdida por eso la prioridad del gobierno se ha fijado

económica con el propósito de reducir esta tasa de paro por debajo del diez por ciento durante esta legislatura

macroeconómico descrito contextualiza un proyecto de presupuestos que además debe tener en cuenta el marco plurianual con sus tendencias económicas y con una senda

que el proceso de consolidación fiscal que afecta a las políticas económicas y presupuestarias

y por tanto también a euskadi limita enormemente la capacidad de agregar ingresos vía déficit

no obstante hay que señalar que el esfuerzo de consolidación que se plantea para el presente ejercicio es moderado ya que el déficit del cero coma seis por ciento es similar al que se produjo al final del año dos mil dieciséis

de que los ingresos provenientes de las aportaciones de las diputaciones no suponen en este ejercicio prácticamente incremento alguno sobre las previstas el ejercicio anterior ahora bien en términos comparativos del presupuesto sobre el presupuesto el nivel de déficit pasa del cero coma tres por ciento el año dos mil dieciséis

y eso es lo que permite el crecimiento moderado de los ingresos que como he dicho en más de una ocasión no permite grandes alegrías en el gasto pero da un margen de actuación importantes decisiones en el marco de las políticas públicas en términos globales los presupuestos generales

contienen dotaciones para atender gastos de la administración pública de la comunidad autónoma de euskadi en la cuantía total de once mil cincuenta y nueve coma siete millónes de euros

y de ciento veintiséis coma cuatro millónes en términos absolutos

informativamente los del propio parlamento desde el punto de vista de los ingresos a las aportaciones de las diputaciones forales para este ejercicio suponen

millónes esto es el ochenta y dos coma tres por ciento de los ingresos presupuestarios totales de la suma de las nuevas necesidades debidas al déficit y la

resultan unas emisiones brutas para este año dos mil diecisiete

millónes de euros la carga financiera para el presente ejercicio

ascenderá a mil treinta y seis millónes de euros de los cuales setecientos sesenta y ocho serán

pago de intereses ambos conceptos experimentan

se sitúa en los ciento cuatro millónes a este respecto

ha venido descendiendo paulatinamente siendo actualmente del dos coma treinta y seis por ciento en lo que se refiere al saldo por operaciones corrientes esto es la diferencia

y los gastos corrientes alcanza los doscientos veintisiete coma cuatro millónes

para generar un ahorro positivo un aspecto que me gustaría porque en contra de algunos malentendidos ello supone por añadidura que la financiación debida al endeudamiento va dirigida a acometer gastos de capital lo que constituye la regla de oro de las finanzas públicas si se analiza el presupuesto desde la perspectiva del gasto siguiendo los capítulos de la clasificación económica los gastos de personal y funcionamiento

la novedad viene en que los gastos financieros que presentan una reducción del once por ciento en términos comparativos por lo que se refiere a la evolución de las inversiones transferencias de capital y aumento de activos financieros se incrementan hasta la cifra de mil doscientos treinta y nueve millónes de euros lo que supone

a los cuarenta y dos coma cinco millónes en relación al año anterior en términos relativos las operaciones de capital se incrementan en un tres coma seis por ciento por encima del incremento del total de las operaciones corrientes

gizarte ekintza en líneas generales la evolución del gasto de las diferentes secciones de los presupuestos refleja la orientación

de actuación garantizar las políticas públicas para la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas y favorecer un crecimiento sostenible que impulse

y el empleo como consecuencia de ello en términos globales el setenta y seis por ciento del gasto del presupuesto del dos mil diecisiete corresponde a políticas sociales salud

planificadora del gobierno acaba de dar inicio a través de la reciente aprobación

por parte del consejo de gobierno del calendario de planes estratégicos de la legislatura que como saben son quince lo cierto es que este proyecto de las cuentas públicas ya incorpora

en algunos planes a confeccionarse y a aprobarse este mismo año

y departamentales vigentes todo ello tiene su reflejo en las principales políticas públicas que a través de estos presupuestos este gobierno tiene previsto

de este año a continuación voy a referirme a las principales cifras de las mismas así por ejemplo comienzo por los cuarenta y tres millónes de euros asignados a la agencia vasca de cooperación al desarrollo para continuar con la labor de solidaridad con los países en desarrollo al objeto de contribuir a la construcción de un mundo más justo y equilibrado el importe dedicado a justicia en el presupuesto del dos mil diecisiete asciendo a ciento setenta y cinco coma uno millónes de euros

a la atención de las necesidades sociales en el ámbito de la justicia y a la articulación de medios alternativos a la resolución judicial de conflictos la política de seguridad ciudadana y protección civil cuenta con un total de seiscientos quince coma cuatro millónes de euros de los cuales quinientos noventa y tres coma seis son destinados a perfeccionamiento y el mantenimiento de la ertzaintza doce coma uno a tráfico

la política de lucha contra la exclusión social contará con un importe total de quinientos treinta y cuatro coma nueve millónes de euros incluyendo los destinados a la renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda cuatrocientos noventa y uno

millónes y a las ayudas de emergencia social con veintitrés millónes de otros cuatro millónes de euros como mecanismo de compensación fijado en la disposición transitoria octava de la ley de instituciones locales de euskadi respecto a la política familiar

sesenta y tres millónes a las medidas para la protección

de la vida familiar y laboral en el ámbito del empleo las políticas activas de empleo tendrán

una dotación de trescientos cuarenta coma nueve millónes de euros de los cuales doscientos veintiocho se dedicarán a la promoción del empleo y ciento doce coma nueve serán dedicados a la formación profesional no reglada por otro lado el servicio vasco de empleo destinará ciento noventa y nueve coma nueve millónes de euros a ayudas a la incentivación del empleo tales como las destinadas a centros especiales de empleo o al programa lehen aukera por ejemplo y noventa y cuatro coma seis millónes a la formación para el empleo donde incluyen dieciocho coma cinco millónes de euros gestionados por lanbide en colaboración con la fundación pública

cuyos presupuestos como entidad del sector público se incluyen por primera vez

para la ejecución de acciones de formación programadas por las empresas y dirigidas a la mejora de las competencias y a las cualificaciones de las personas trabajadoras el presupuesto previsto para el desarrollo de la política de salud asciende a tres mil quinientos treinta y siete coma cinco millónes de euros ciento dieciséis millónes de euros más que en el ejercicio anterior en dicho importe se incluyen

millónes destinados a los contratos programa del departamento de salud con las veintidós organizaciones de servicios de osakidetza

además para garantizar que el sistema de salud cuente con la tecnología e infraestructuras adecuadas se van a destinar cincuenta y dos coma seis millónes de euros a la afinación de inversiones de osakidetza fíjense euskadi invierte mil seiscientos diecisiete euros al año por persona en salud

superior a los quinientos millónes de euros así mismo estos presupuestos destinan

millónes para avanzar en la equidad y en la calidad del sistema educativo

en estas etapas son por un lado las correspondientes a las necesidades básicas de funcionamiento de la red pública

incluye gasto de personal de funcionamiento obras en centros educativos

y equipos para procesos de información y por otro los seiscientos nueve coma siete millónes que se destinan al pago de los conciertos educativos en los centros

de cuarenta y dos coma siete millónes a la vez que se subvencionan la oferta privada

igualmente se destinarán cuarenta y cinco coma ocho millónes a la formación permanente e innovación educativa del profesorado en el capítulo de enseñanza superior

hacia la excelencia internacional del sistema universitario vasco con un montante de trescientos diecisiete millónes de euros durante este ejercicio seguiremos apoyando el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación

y en los centros de investigación básica de excelencia así como las políticas de captación promoción y retención de talento incrementando anualmente un cinco por ciento los recursos destinados a la política científica a la investigación universitaria básica

hacia un escenario futuro de gasto en la enseñanza superior del uno coma cinco por ciento

además este año se prevé transferir una parte de la financiación por objetivos a la financiación ordinaria de la universidad pública para así consolidar parte del personal y cumplir con los acuerdos establecidos en el plan universitario en el ámbito de la promoción educativa por último se destinarán un total de ciento setenta y tres coma nueve millónes a becas y ayudas universitarias y no universitarias

escolar las políticas en materia de medio ambiente a su vez cuenta con cerca de ciento noventa y dos millónes y ha experimentado un incremento de doce coma nueve millónes respecto al año dos mil dieciséis

en la ley de vivienda para facilitar el acceso a una vivienda digna

especialmente a quienes se encuentran en situaciones de exclusión social

este ejercicio dos mil diecisiete con un presupuesto de ciento ochenta y nueve coma siete millónes de euros

de programas de promoción de cultura patrimonio histórico artístico medios de comunicación social

se destinará una cantidad de cincuenta y dos coma tres millónes de euros

en el programa de normalización lingüística de la administración pública otros diez coma tres millónes

del sistema educativo cuarenta y dos coma cuatro millónes de euros para el

la política de transportes e infraestructuras asciende a un total de seiscientos treinta y cuatro millónes de euros contemplando un crédito presupuestario para la ejecución

la y vasca de trescientos cincuenta coma cinco millónes

el presupuesto de dos mil diecisiete con una dotación de doscientos sesenta coma cuatro millónes de euros supone la plasmación del tercer año de vigencia del nuevo plan de ciencia tecnología e innovación dos mil veinte

con ciento treinta y nueve coma nueve millónes de euros desempeña el papel más importante en términos económicos para impulso de la estrategia de especialización inteligente de acuerdo con el modelo europeo de ris tres

dotado para el dos mil diecisiete con cuarenta y cuatro coma tres millónes de euros anualmente el cinco por ciento de los recursos destinados a la política científica y a la investigación básica universitaria tal y como he señalado

contará con diecisiete coma siete millónes de euros

que afecta a varios departamentos dispondrá de treinta y siete millónes de euros la agenda de innovación digital con carácter también trasversal está dotado con veintiuno coma seis para financiar actividades de fomento y extensión

de euskadi dos mil veinte y los kzgunea en el gasto

ganadería y pesca alcanza a ciento trece coma cinco millónes de euros de los cuales sesenta y uno coma uno provienen de fondos europeos en relación con las políticas orientadas a mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento económico vamos a seguir incidiendo

los efectos de la crisis sobre las empresas vascas y reforzar

del tejido económico como medio para mejorar permanente y sosteniblemente nuestro bienestar a su vez se va a seguir fomentando

e impulsando la internacionalización de las pymes estas políticas para el presente ejercicio suman un importe total de ciento treinta y uno coma siete millónes la política energética por su parte está protagonizada por el ente vasco de la energía con un presupuesto que asciende a los treinta y siete coma dos millónes de euros

en dos mil diecisiete alcanzará los diecisiete millónes de euros y por su parte la política pública de comercio del gobierno vasco se desglosa en dos ámbitos el comercio interior

millónes de euros respectivamente estas son las principales cifras de unos presupuestos

y de los grupos que lo sustentan hemos tratado de consensuar y acordar con los grupos de la oposición

hemos mantenido como saben reuniones con todos los grupos parlamentarios de la cámara con una actitud totalmente abierta como punto de partida y en contra de lo que se haya sugerido por algunos sin prejuicio ni actitud

ha sido a través de estas conversaciones como hemos ido descubriendo algunas aproximaciones

y también discrepancias de diferente calado que en algunos casos llegaban a chocar con las bases del modelo presupuestario

ideologiaren ikuspegitik en particular en las sucesivas rondas de contraste de ideas con euskal herria bildu y elkarrekin podemos hemos constatado que dichos grupos

ostensiblemente del proyecto de presupuestos aunque ello no impedía que pudiéramos compartir el análisis de ciertos aspectos de la actual situación lo cierto es que las discrepancias políticas y económicas de concepto y de forma afectaban

sin duda es totalmente legítimo y lógico que afloren estas diferencias ya que responden al clima ideológico y a la personalidad de cada grupo y a la forma en que cada uno

simplemente hemos llegado hasta un punto en el que no parecía posible una convergencia real por el contrario hemos encontrado que el partido popular no impugnaba los pilares básicos del modelo de presupuestos del gobierno y eso es lo que ha permitido un diálogo dirigido a proponer

reforzados así ha ocurrido con las políticas dirigidas a la mejora de nuestro tejido económico al emprendizaje y a la pequeña y mediana empresa a las inversiones y al apoyo a determinados servicios esenciales como la salud

algunos relevantes además de ello hemos coincidido

y que ese era un valor que merecía un esfuerzo de acercamiento alderdi popularrekin ere bildu gara eta hainbat alor hobetzera bideratutako

bi alderdiek por ello aún desde

de notables diferencias políticas ideológicas y económicas por ambas partes hemos visto que era posible compartir con el partido popular del país vasco un diagnóstico común

a reforzar algunas políticas públicas de interés incorporando determinadas iniciativas que no desvirtúan en mi opinión el proyecto presentado por el gobierno

me gustaría subrayar y agradecer al mismo tiempo la predisposición al diálogo y acuerdo de todos los grupos parlamentarios con los que hemos contrastado al menos nuestras prioridades

voluntades para garantizar este presupuesto lo que como consejero de hacienda y economía y responsable de los presupuestos agradezco sinceramente

quiero poner en valor no solo el acuerdo sino también el esfuerzo de la totalidad de las fuerzas políticas

de los grupos que apoyan al ejecutivo del grupo euzko abertzaleak y socialistas vascos de los que recibiremos el apoyo principal

también quisiera señalar que se trata del primer presupuesto de esta legislatura y aunque pueda parecer que nace como un presupuesto de transición en lo económico

no resulta igual desde la perspectiva política este es un presupuesto que nace de un ejecutivo formado

con un programa de gobierno para la presente legislatura exhaustivo y con las prioridades económicas y presupuestarias muy claramente marcadas

sino porque a lo largo del año dos mil diecisiete se van a producir

en el primero por la evaluación de la reforma fiscal que entró en vigor el año dos mil catorce que se está haciendo y por las medidas de actualización que se pudieran proponer en el terreno de las

de ejercicios anteriores así como la metodología de señalamiento mismo para el presente

podemos decir que durante el presente ejercicio se pueden llegar a asentar las bases de unas nuevas perspectivas económicas para los próximos años que se pueden resultar

el crecimiento económico y la cohesión social me gustaría pensar sinceramente que vamos a ser capaces de superar las exigencias del proceso de consolidación fiscal

y que vamos a ser capaces de hacer realidad estas nuevas perspectivas el gobierno desde luego pondrá en ello su mejor empeño y espero contar sinceramente con

egun on guztioi el objetivo del pleno de hoy es debatir sobre la aceptación o no de los presupuestos presentados por el gobierno para el ejercicio de dos mil diecisiete empezaré sin rodeos nos encontramos ante un presupuesto malo

y que además va a ser aprobado a través de un mal acuerdo un presupuesto cuantitativamente malo porque está basado en una base recaudatoria insuficiente que es incapaz

un presupuesto cualitativamente malo porque selecciona mal las prioridades desaprovechando las oportunidades que a pesar de lo limitado de los ingresos siempre ofrece disponer de un volumen

por la forma porque ha sido pactado en secreto y fuera de nuestro país por el fondo porque ha sido acordado con el partido popular la fuerza que más rechazo genera en nuestra tierra por su política de recortes en derechos y libertades

su vinculación a la corrupción su negligente gestión económica su oposición al proceso de normalización en euskal herria y su negativa a reconocer los derechos de este pueblo

un presupuesto de mera gestión fruto de la mentalidad conformista y autocomplaciente del gobierno un presupuesto que confunde realismo con resignación

entre las ambiciones irrealizables y la pura pasividad hay un punto aristotélico de equilibrio

un gobierno con perspectiva estratégica sin limitarse a ser notario de la realidad existente un gobierno con vocación de progreso debe aspirar a ser coparticipe junto al conjunto de la sociedad en la construcción de una realidad mejor topikoak dio aurrekontuak direla gobernu batek bere asmo politikoak

atraviesa serias dificultades la meta el objetivo de país que este gobierno se ha propuesto es reducir el abandono escolar al menos del ocho por ciento si consultamos la epa

pero si vamos al eustat nos señala que estamos en el siete coma dos hau da helburu hori

en el ámbito de la paz el objetivo perseguido por el gobierno será el desarme de eta

teniendo en cuenta que desde diciembre del año pasado es público y notorio que tal proceso ya está en marcha y que su culminación en un breve plazo de tiempo es solo una cuestión técnica

están seleccionados por el propio gobierno como los estandartes de esta legislatura quince objetivos centrales cuya ambición y rigor estamos comprobando

estratégicos de innovación pueden ser cien diez o mil da igual

o en otros indicadores como patentes o publicaciones no

un objetivo sin sentido más fuegos de artificio sobre todo si luego pasa

al que entre el gobierno vasco y el gobierno español están dejando morir por inacción presupuestaria o quizás estos investigadores

que los investigadores predoctorales en la más absoluta precariedad

según eustat en dos mil quince el dato estaba en el veinticuatro por ciento sigamos

y aquí nuevamente hay truco no nos dicen que en dos mil catorce último año con cifras de eurostat ya estábamos en el ciento diecinueve y que tanto en dos mil quince como en dos mil dieciséis

han sido superiores a la media europea por lo que estamos ya probablemente

ehuneko hamaretik jaistea izango da laboral kutxa en un informe presentado el pasado diciembre aún sin constituirse este gobierno prevé que para este año la tasa de paro ya baje al once por ciento esta misma entidad publicó otro informe febrero dos mil dieciséis

los puestos de trabajo a cubrir por la demanda de sustitución es decir por motivos de jubilación

parece por tanto salvo reversión del ciclo económico una cuestión más demográfica

acumular partidas de diversos departamentos y multiplicarlas por cuatro para dar la impresión de que se activa una gigantesca cantidad de dinero como ha hecho el gobierno con su plan de empleo es un recurso propagandístico

nada nuevo podrá alegarse que a pesar de todo el país avanza y que los principales indicadores van mejorando es cierto en algunos aspectos pero hay que hacer dos aclaraciones

que es el gran secreto de la bonanza relativa de la economía vasca y además se basa también en la recuperación del entorno al que el propio consejero se refería con la expresión viento de cola recuperación del entorno económico global

precio del petróleo el abaratamiento del dinero la bajada del euro

de los mercados exteriores mejoramos aquí sí mejoran en españa mejora en europa se mejora en todo el mundo bestalde

casi se puede decir que hace trampas presentando objetivos que prácticamente están logrados para poder luego presumir de que cumple sus promesas y si algo sale mal de forma que no se puede ocultar siempre les quedará el comodín de la comparación con españa que seguramente estará peor calificar a este gobierno como anodino y pasivo no es un mero tópico de la oposición

a la vista de que sus propuestas estrellas para la legislatura consisten en no retroceder o avanzar un poquito

una legislatura casi en blanco es otra muestra de la pasividad de este gobierno permanentemente en funciones gobernu programaz hitz egiten hasi dut hitzartzea hain zuzen ere

participó en un acto con la patronal vasca para explicar conjuntamente los datos de un estudio y su compartido diagnóstico de la evolución de la economía y el empleo

comparecieron en este acto acompañados por tres consejeros cuatro viceconsejeros y seis representantes de sea cebek y adegi algún malpensado diría que esto es casi el gobierno en pleno

y que quienes estamos en la realidad y trabajando en la realidad para que sea mejor somos la administración y creo que también las patronales no sé cómo son las cosas

todos los sindicatos todos han venido a esta cámara en los últimos días a denunciar que confebask ha bloqueado la negociación colectiva para aplicar una bajada de salarios

aprovechándose para ello de las reformas laborales impuestas por su socio de gobierno y por su nuevo socio presupuestario fruto de ello los trabajadores y trabajadoras de este país

es decir son un cinco por ciento más pobres a pesar de las flamantes

voy a dar una serie de datos que sí forman parte de la realidad de la mayoría de la gente de este país

ante estos datos complejos de una realidad socioeconómica compleja para una mayoría no hay objetivos de país para resolverlos mutis por el foro y es que darle la vuelta a esta realidad sí que es difícil

determinación y recursos y este gobierno parece carecer de ellos los presupuestos sería la forma adecuada de transformar esta realidad los aspectos más negativos de la misma o al menos intentarlo pero la realidad paralela urkullu confebask

durante todo el debate presupuestario eh bildu ha sostenido tres principios claros en primer lugar manifestamos nuestra voluntad de entablar una negociación real con el gobierno sobre estos presupuestos para tratar de mejorarlos hablábamos

para explorar la posibilidad de acuerdos sin quedarnos en la descalificación global de un presupuesto que podría haber sido rechazado sin más por nuestra formación

lo hacíamos porque entendemos que en este país sin mayorías absolutas los gobiernos deben tener la posibilidad de dialogar con la oposición para buscar acuerdos y porque no vamos a practicar una oposición de bloqueo basada en el no sistemático sino que queremos desarrollar una acción constructiva cuyo sentido no sea oponerse apriorísticamente a todo lo que hace el gobierno sino tratar de ser útiles para mejorar las cosas y la vida de la gente

habrá que rechazarlas incluso con firmeza y en otros casos habrá que explorar las posibilidades de acuerdo además de plantear esa voluntad sincera de diálogo

el presupuesto ofrece una subida nominal de un uno coma dos por ciento

según el ine el año pasado la inflación subió un uno coma cinco por ciento en esta comunidad

relacionando a estos datos llegamos a la conclusión de que los presupuestos pierden tanto poder adquisitivo

que van en la dirección contraria de lo que debe suceder en un país desarrollado el problema reside en el fracaso de la política fiscal en vigor

ante esta realidad caben dos posiciones la del consejero de hacienda señor azpiazu cuando dice esto es lo que hay y que vamos a tener unos presupuestos ajustados hasta dos mil veinte o la de eh bildu compartida a nuestro entender con una amplia mayoría social cuando décimos que hay que hacer una profunda reforma fiscal solo esta segunda es realista y responsable el año próximo nos va a tocar pagar trescientos millónes más en concepto de deuda el límite de déficit se reducirá al cero coma tres por ciento lo que supondrá otros doscientos millónes menos sin incluir el efecto de la inflación en dos mil dieciocho vamos a contar de inicio

casi un cinco por ciento menos en el presupuesto díganme entonces

escondiendo los problemas hasta el año que viene cronificando la insuficiencia de recursos o plantear que se deba debatir también este año sobre los ingresos

ez eajk esan digu ez ez eta ez y hablo del pnv ya que es la única voz en este gobierno

el paso del no es no a rajoy al sí es sí a rajoy

y sí a rajoy como socio presupuestario en gasteiz decía que el pnv nos ha dicho no a todas nuestras propuestas no ha querido negociar con eh bildu porque estaba negociando en secreto en madrid con el pp no ha querido comprometerse con una reforma fiscal

y no han querido negociar la reordenación del gasto porque fruto del pacto secreto con el partido popular de madrid tenían un compromiso para que este partido

a cambio de no sabemos muy bien qué contrapartidas pero que en cualquier caso esas contrapartidas

porque el pnv no las confiesa ignoro si el apoyo a los presupuestos de rajoy por parte del pnv ya está cerrado pero es obvio que está encima de la mesa

que montoro ha anunciado que va a aplicar a la ciudadanía del estado español entre la que de momento desgraciadamente y hasta que no le pongamos remedio también nosotros y nosotras nos encontramos con esta decisión el pnv no solo se convertiría en cómplice de esos recortes sino que además daría estabilidad a un gobierno denostado por la inmensa mayoría de la sociedad vasca es normal que en pnv estén nerviosos y recurran a argumentos para justificar un acuerdo con el pp que a la mayoría de la sociedad le resulta injustificable todo el país sabe que los acontecimientos han sido tal y como los he contado

todo el mundo por eso les pido que traten de justificar sus decisiones sin recurrir a la mentira ni a la descalificación que dejen de inventarse historietas con tinte de culebrón que describen al pobre pnv obligado por eh bildu a pactar con el pp

dejen de mentir porque está feo y además mentir cuando todo el mundo sabe que se está mintiendo les pone en una posición

defiendan que su apuesta es por el partido de los recortes de la corrupción de la negación de los derechos de este pueblo defiendan que están con el único partido

defiendan que se apoyan en un partido que ha utilizado de forma irresponsable la xenofobia

en la superación de sus principales carencias pusimos sobre la mesa la imprescindible reforma fiscal que ampliara la base recaudatoria para dar al gobierno los recursos necesarios para desarrollar las políticas públicas de prestación de servicios y promoción económica izan ere

ez izatea por otro lado eh bildu solicitó una amplia reordenación del gasto

el fortalecimiento de los servicios públicos y la protección social el rechazo del pnv a entrar tan siquiera

nos ha obligado a convertir estas propuestas en enmiendas han sido doscientos noventa y cuatro las enmiendas presentadas por nuestra formación por un valor total de seiscientos siete millónes de euros

a movimientos de partidas ochenta a créditos de compromiso y trescientos cincuenta a la reorientación de los recursos destinados al tav hacia un plan de renovación y transferencia

el debate sobre las enmiendas parciales nos dará ocasión de hablar con más detalle de estas propuestas e igualmente profundizaremos en el análisis técnico del proyecto presentado por el gobierno pero avanzaré a continuación las principales ideas formuladas por eh bildu tenidas en cuenta la creación de empleo tanto en el sector público como en el privado ha sido la auténtica prioridad para nuestra formación por un lado hablábamos de recuperar mil doscientos empleos en sectores tan importantes como la sanidad o la educación

que han sufrido estos servicios públicos en los últimos años también proponemos un plan de empleo verde unido a una estrategia para la transición hacia energías renovables creemos que el fortalecimiento de la industria es esencial para la generación de empleo también en el ámbito privado

y que se apueste por el desarrollo de las comarcas más desfavorecidas dos viejas reivindicaciones de eh bildu que el gobierno dice asumir en su programa pero que se le ha olvidado

varios años tres años consecutivos de descensos entre las doscientos setenta y seis unidades estadísticas europeas conocidas como

mientras esta comunidad se encuentra perdida casi en el puesto cien no vale decir que se amplía el presupuesto en investigación un cinco por ciento incremento que por cierto

no ha sabido o no ha querido desglosar a este parlamentario en respuesta a una pregunta escrita de dónde salen esos incrementos y esos totales que ofrece el gobierno es necesario ir más allá es necesario articular una dinámica para sintonizar todas las sinergias socioeconómicas necesarias

es estratégico nos jugamos el futuro y en ese sentido hemos presentado una enmienda

renegociar la deuda miles de millónes que generan una fuerte cantidad solo en concepto de intereses no tiene sentido que una comunidad que está emitiendo bonos a tasas de interés negativa esté pagando deudas a tipos de interés de otra época podrían ahorrarse al menos veinte millónes y es una cifra muy prudente si se pusiera en marcha

renegociación y en su caso de sustitución de la deuda por la que se están pagando mayores intereses también es necesario abandonar las políticas de explotación de gas

para embarcarse de pleno en una dinámica de transición hacia las energías renovables igualmente

cuestionables y cuestionadas para centrarse en aquellas cuya realización suscita un mayor acuerdo se puede ahorrar en seguridad privada en propaganda en software privativo en altos cargos se pueden liberar una cantidad importante de recursos

a las áreas realmente prioritarias se puede hacer y eh bildu lo ha hecho en sus enmiendas demostrando empíricamente que es posible mejorar y mucho este presupuesto

eskatzen dugu proponemos establecer una moratoria sobre el tav una infraestructura sobre la cual ni el más entusiasta de sus

que es urgente ya que su teórica justificación las conexiones de media distancia no están aún construidas ni tienen visos de acometerse a corto plazo la moratoria en la construcción debiera complementarse con un pacto de infraestructuras con el estado

por encomienda de gestión posible legal y mejor un acuerdo que solo dependería de la voluntad política de las partes y que podría poner fin al estado de abandono en el que se encuentra algunas de las principales infraestructuras de titularidad estatal de nuestra tierra siempre en el marco de transferencia de las mismas en lugar de hacer un tren para ricos

que mejoran la vida de la mayoría y contribuyen a facilitar un desempeño económico de esta comunidad soterramientos de trazados pasos a nivel seguros estaciones modernizadas aeropuertos mejorados y coordinados puertos más eficientes e integrados en sus entornos

que deberían culminar en la plena transferencia de estas infraestructuras cuestión ampliamente demandada por esta sociedad uste dut demostratuta geratu dela

o mirar a madrid y a la derecha el pnv ha elegido mirar a madrid y a la derecha esperemos que este acuerdo con aroma de gran coalición no sea el inicio de una decantación estratégica tras las elecciones propusimos al pnv conformar un gobierno de base amplia para afrontar los retos

el más importante de los cuales es construir un nuevo status político basado en el derecho a decidir nos dijeron que no

su viabilidad en años futuros mediante una reforma fiscal y nos han dicho que no han elegido al pp amaitzen joan bai amaitzen ari naiz para pactar con eh bildu hace falta un debate sobre contenidos un acuerdo político real

pero el pnv se encuentra más cómodo buscando muletas que socios por eso recurre al acuerdo fácil

eso es mirar a corto plazo no sé qué tipo de país quiere construir el pnv con el psoe y el pp

quizás no tenga ninguna intención de construir país y solo aspiran a seguir instalados en la atalaya de su poder institucional pactando para ello con el poder político y económico español
eskerrik asko sí ya estoy terminando

por muy crispado y tenso que esté el clima político siempre podremos decir que hace unos años la cosa estaba peor

con serenidad no damos nada por imposible ninguna relación por rota ningún puente por quebrado gaur aurrekontu hauekin zein hauei bide emateko

muchas gracias señora presidenta la verdad es que

porque está claro que nuestros modelos de sociedad son absolutamente distintos y divergentes lo que pasa es que hay algunas palabras que usted usa

o la prohibición a los ciudadanos en todo y puede aplicarlo a lo que usted quiera y nuestro modelo es muy distinto no se basa en territorios nuestro modelo se basa en las personas que son los sujetos de derechos

en la iniciativa privada en que la administración en este caso el gobierno vasco debe estar al servicio de esos principios

que la mejor expresión de libertad individual es tener un trabajo estable y de calidad

cuando dispone de recursos propios y no cuando está subvencionado ya sé que a ustedes les gusta el otro sistema a nosotros no

que no dependa de ninguna administración eso es lo que nos gusta

las igualdades por arriba y evidentemente defendemos la libertad de opción que es parte de la libertad

y ese es nuestro modelo que se difiere muy mucho del suyo y por eso evidentemente

y otros estamos en otro y es el gobierno el que debe garantizar la igualdad de oportunidades y no es la fiscalidad la que redistribuye la riqueza la fiscalidad es el gobierno el que debe redistribuir la riqueza

y que en la fiscalidad paguen los más ricos que los que más ganan paguen más

todos ustedes al club de la constitución española del año setenta y ocho que ya lo recoge y es obligatorio haciendo así desde aquel año desde que se impuso el primer

en españa claro la política fiscal debe garantizar el estado de bienestar social

como ustedes aplicaron en parte en gipuzkoa cuando gobernaron y además debe favorecer eso que nosotros le hemos dicho que es la principal

debe favorecer que haya ahorro debe favorecer que haya inversión

no son ustedes o el gobierno el que va a crear el empleo el empleo lo crean los empresarios y por lo tanto por lo tanto

planteamos al gobierno que tenía que elegir un modelo y un socio lo decíamos muy en serio y cuando ustedes nos hablan de deuda de deuda señor casanova nosotros le tenemos que decir que nosotros sí queremos estar en la unión europea

avance y queremos estar en el euro y que el euro avance y queremos cumplir los requisitos que exigen de déficit sí y aunque no estuviéramos en el euro y aunque no estuviéramos en europa

usted no se endeuda porque sí verdad claro no usted no le gusta pagar intereses a los bancos porque sí verdad

amolda los gastos a los ingresos claro pues las administraciones deben hacer lo mismo las administraciones no pueden

sufren los ciudadanos esa política y evidentemente nuestro modelo también ahí es muy distinto

usted que es tan amante de la deuda del gobierno verdad por lo visto no la pagamos los ciudadanos las deudas de los gobiernos no se preocupe que ya sabe usted que la partida más importante de este presupuesto de este gobierno y del que vienen y del que viene es el pago de la deuda

un diez por ciento del presupuesto y usted

lo que nos interesa y nosotros preferiríamos que esa partida disminuyese y que los ingresos fiscales sirvieran para financiar otras cosas

muy distinto y desde luego la mejor política social

la mejor política social es la contraria es la que como se crea empleo y hay más empleo

refleje mucho más dinero en esas partidas para nosotros es malo

de una muy mala política en la creación de empleo pero ustedes claro qué no se han planteado ustedes nos plantean que hay que subir

lo que nos han planteado en su presupuesto eso son cuarenta y cinco millónes de euros más

claro y luego nos dicen ustedes que es que bueno

usted sabe que no es posible que si no son para el ave no hay trescientos cincuenta millónes con lo cual

fajo de enmiendas que nos ha dicho que han presentado y que se financian contra esa partida sabe que es falso que es falso son enmiendas falsas

por lo tanto ustedes nos han presentado unas enmiendas y unos presupuestos

no van por donde nosotros planteamos no reflejan la prioridad que nosotros tenemos que es el apoyo a la creación de empleo y eso es apoyo a las empresas que son las que crean empleo

que es lo que nosotros apoyamos y que se reflejan en el acuerdo al que hemos llegado y señor casanova esto de que usted pedía aquí respeto y que no se insulte creo que nos ha lanzado a nuestro grupo varios insultos gratuitos no sé por qué pero

no es en nuestro grupo donde se sienta gente con antecedentes penales por terrorismo no es en nuestro grupo

es en el suyo donde se sientan cuando me habla de artesanos de la paz mire

la guardia civil tiene la medalla de oro se la pusieron ustedes hace mucho tiempo y le tengo que decir que cuando se pacta uno tiene dudas

gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días estos son los primeros presupuestos de la nueva legislatura y los socialistas vascos los apoyamos porque son el instrumento económico que junto con las políticas acordadas entre partido nacionalista vasco y el partido socialista van a permitir apuntalar

empleo estable y de calidad y son también unos presupuestos para la solidaridad y para la cohesión social presupuestos que aseguren el mantenimiento de las políticas públicas y de la protección social y que pretenden mostrar el compromiso y la responsabilidad

con la sociedad priorizando la agenda social y la igualdad de oportunidades para la ciudadanía vasca estamos en contra de la enmienda a la totalidad de bildu porque supone perder este año dos mil diecisiete un tiempo valioso cuando las prioridades y los retos estratégicos y políticos para esta legislatura

en un acuerdo de gobierno y también en un programa cuyo desarrollo y ejecución a través de planes de acciones concretas no puede esperar señor casanova a que algunos desojen la margarita o no a la negociación esta enmienda a la totalidad de bildu no supone unos presupuestos alternativos que propongan otro modelo económico y social diferente al que está planteando

la enmienda propone la devolución de los presupuestos del gobierno basándose en unas premisas y declaraciones que no compartimos en absoluto y no porque hayamos sucumbido a la autosatisfacción y creamos que estamos en la arcadia feliz no estos son unos presupuestos que desde su origen consolidan derechos sociales

y nuevas formas de protección ante nuevos fenómenos de riesgo de exclusión como son el derecho a la vivienda o la atención a los casos de pobreza energética esto es la prueba de que la constancia en política es un gran valor porque los acuerdos presupuestarios suscritos por los socialistas la pasada legislatura hoy son en estas cuentas una realidad de facto y nos parecen razones sobradas y de peso para que este presupuesto se haga realidad cuanto antes

euskadi dos mil veinte para esta legislatura por eso señor casanova rechazamos la enmienda

porque no es verdad que no se hayan planteado unas políticas públicas fuertes porque no es verdad que haya una falta de estrategia

sea más de lo mismo y todo muy previsible salvo la flexibilidad de europa en el cumplimiento del déficit y el agujero que se generaron en los ingresos de dos mil dieciséis

porque una cosa es cargar las tintas en los argumentos y otra cosa es tirar el tintero

estamos en contra de la enmienda a la totalidad de bildu porque una prórroga presupuestaria retrasaría y haría inviable la puesta en marcha de políticas planes y reformas legales

para afrontar la salida de la crisis con determinación políticas como el programa marco por el empleo y la reactivación económica que busca reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento en euskadi que es una estrategia de país con entre otras cosas una línea específica de apoyo al empleo juvenil para dar una oportunidad al empleo

su presentación un trimestre y porque no podemos perder señor casanova ni un solo minuto en dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía es por lo que vamos a debatir este año

dos presupuestos la enmienda de bildu tacha al gobierno de haber perdido

y nada más lejos de la verdad los socialistas compartimos con los nacionalistas vascos un programa de gobierno para esta legislatura que sin duda tendrá efectos

no solo a medio plazo sino también más allá del año dos mil veinte los socialistas hemos apostado por el acuerdo con diferentes para sacar al país adelante pero es hora de que ya bildu se aplique el cuento y adopte decisiones estratégicas de mirada larga lo que en su día fueron pactos en esta cámara trasladados a enmiendas socialistas hoy ya son compromisos de gobierno hoy son compromisos presupuestarios consolidados la enmienda socialista pobre pobreza energética ha permitido a dos mil ochocientos diez familias

ni de agua hoy la ley de vivienda y su desarrollo efectivo se garantiza

después de que seiscientos diez familias hayan accedido a una vivienda de la que no disponían antes del año dos mil dieciséis gracias a que evitamos la devolución de las anteriores cuentas presupuestarias y ahora señor casanova es posible atender a nuevos colectivos y destinar además el ochenta por ciento de los presupuestos a la vivienda de alquiler

no solo está de saque en este proyecto de presupuestos sino que tiene un incremento del seis por ciento para los socialistas es un orgullo poder decir que aquello con lo que nos comprometimos aquello en lo que fuimos capaces de buscar puntos de acuerdo con otros grupos lo hemos transformado en realidades tangibles

y por eso sinceramente nos cuesta entender que quienes participaron de aquel esfuerzo del consenso en esta cámara se descuelguen del acuerdo presupuestario

y además lo hemos elevado a compromiso de gobierno por eso y no porque hayamos caído en la autocomplacencia no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad de bildu sí entendemos que a quienes hoy piden la devolución de los presupuestos les habría gustado ir a más

también por eso decidimos influir señor casanova los socialistas formando parte del gobierno en esas decisiones que se adoptan en el año dos mil diecisiete y en las que se adopten a lo largo de estos cuatro años y sobre todo

para afrontar las próximas décadas y para eso hacen falta los presupuestos

para abordar también el futuro pero para esas luces largas que hemos echado en falta

porque en noviembre no cerramos los socialistas un acuerdo de gobernabilidad pensando en cómo transitar en estos cuatro años sino en cómo cimentamos la transformación que estaba pendiente

puedan seguir contando con una sanidad pública con una educación pública y con una protección social que no abandone a nadie que no deje a nadie en la cuneta y que podamos promover

empleo de calidad y oportunidades para quien hoy no las tiene

ofreciendo un marco de estabilidad muy necesitado en un entorno muy convulso aquí en euskadi en españa y en el mundo y esta es la clave de lo que hacemos

ni de sus sentimientos ni de su identidad y creemos que hay quien todavía medio año después

en el escenario inédito que se abre en euskadi en esa clave hemos entendido la enmienda de bildu pero en euskal herria bildu más que una enmienda a la totalidad lo que vemos es una enmienda cargada de escusas

del minuto en el que sintieron el vértigo sobre su posición como primer grupo de la oposición que mira de reojo a elkarrekin podemos no se entiende de otra forma

en torno a la necesidad de la reflexión fiscal en la que ya estamos comprometidos y ustedes lo saben y que hoy hayan encontrado otra excusa que no es la que utilizan

posición que adoptaron en el ayuntamiento de vitoria bildu a pesar de su experiencia institucional

cómo ser el grupo imprescindible de la oposición ni cómo diferenciarse en esa oposición los socialistas seguimos creyendo que desde la oposición se puede influir pero no gobernar y no entendemos que a bildu no le parezca serio negociar un compromiso en torno a la fiscalidad

que no le parezca serio negociar unos compromisos en políticas públicas compartidas en cualquier caso les tengo que decir

lamentamos que los cálculos de estrategias partidistas ajenos a los intereses de la ciudadanía hayan entrado en juego en la negociación de los presupuestos de euskadi y la hayan anulado en lo que a bildu se refiere los socialistas esperamos que todas las políticas públicas que van a ser posibles con estas cuentas puedan mejorarse con aportaciones constructivas y realistas de los demás grupos sobre todo porque hay que abordar grandes reformas que están pendientes

son legítimas y respetables pero yo creo que bildu no ha sabido engancharse al tren de la oportunidad que se está abriendo en euskadi más allá de necesidades numéricas para sacar adelante unos presupuestos una proposición no de ley o cualquier iniciativa los socialistas vascos reiteramos nuestro compromiso expreso por abrir un tiempo nuevo de acuerdos entre diferentes

y señor casanova la dificultad de los socialistas vascos

en el discurso de la falta de valentía de bildu en la falta de priorización de los intereses de la ciudadanía vasca a los intereses partidistas de bildu en la oposición nada más y muchas gracias

a la selva de la negociación ez duzuna esaten da

los que han generado la deuda que en estos momentos tiene esta comunidad son ustedes el gobierno que ustedes apoyaban

si toda la deuda que tiene esta comunidad viene de ahí del momento que ustedes estaban apoyando al gobierno luego hablaríamos en qué condiciones se generó ese gobierno y por qué no tenía capacidad de generar recursos de otra manera pero la deuda es suya

el endeudamiento se hace en función de las posibilidades que uno tiene de responder efectivamente salvo en el caso nuestro

porque esta comunidad tiene capacidad de una forma solvente y sin poner en riesgo nada para asumir un nivel mucho mayor de deuda para responder a necesidades urgentes

ajustada a las posibilidades sí a nuestras posibilidades no a las del estado español que está castigado por europa por la negligencia de su gestión económica y la del gobierno que les precedió y al partido socialista también le tengo que decir que también tiene un papelón

pero el psoe porque sin comerlo ni beberlo tiene que defender algo en los que ellos y ellas

han sido convidados de piedra de una negociación que se ha gestionado fuera de esta cámara fuera de este país como decía y en la que ustedes no han podido tomar parte en absoluto

los sapos del sí es sí sí a rajoy en madrid y sí a rajoy en gasteiz los sapos de que ustedes

encendidas declaraciones para construir alternativas sociales en vez de estar junto con elkarrekin podemos y con eh bildu alineados

son el partido popular y el pnv es decir la derecha qué pintan ustedes ahí

no el problema de eh bildu eta egibar jaunari

es que ppk oparitzen zigun hombre pues hori da pues hasi hortik

de haciendo que es podríamos decir el extraño caso del doctor azpiazu y mister hyde es una reformista fiscal

lo digo con afecto porque lo único que se puede destacar de los contactos que hemos tenido es pues eso la cordialidad entonces él cuando le preguntan hay que hacer una reforma fiscal sí para recaudar más claro

porque recaudamos de forma insuficiente y por tanto si hay que hacer una reforma fiscal para recaudar más

para recaudar más sino con quien propone no hacer una reforma fiscal bloquear un reforma fiscal por qué pasaban por allí y se han ofrecido esa es su visión estratégica ese es su liderazgo de país desde luego y en todo caso por lo menos

a responder un poco al discursos que han venido manteniendo hasta ahora que ustedes no querían

han salido poco de su zona de confort hombre yo no sé si hemos salido poco o mucho

pero ustedes se han quedado en el sofá se han quedado en el sofá fumándose un puro

yo tampoco me creo que se lo hayan regalado no me lo creo no me lo creo y hay páginas y páginas de periódicos que están describiendo la relación que la están adjetivando el flirteo el deshielo

el que ha anunciado en bruselas que iban a apoyar a los presupuestos entonces cómo no vamos a pensar

el debate casi casi está concluido porque es tan evidente lo que ha pasado

no sé si está pactado yo lo que no sé no lo afirmo no sé si está pactado ya su apoyo

lo que nos lleva a decir por lo que se dice y por lo que se induce de lo que se hace que efectivamente hay un proceso para ello hay un proceso para ello entonces ustedes tendrán que decidir cómo país a dónde quieren ir qué proyecto económico tienen qué modelo fiscal tienen

es que cuando le décimos que ustedes no tienen visión estratégica que ustedes son conservadores que ustedes les da igual arre que so con tal de que el partido nacionalista vasco esté en las próximas cuotas de poder institucional

pasa el partido popular por aquí pacto con el partido popular y eh bildu qué pasa qué le pido cosas imposibles no pero me pide cosas

akordio marko bat bai bai bai hay un marco de acuerdo con el pp

porque las cosas fueron así porque es imposible con las premisas que eh bildu ponía encima de la mesa era imposible llegar a un acuerdo en los plazos que el señor azpiazu nos estaba marcando

era precisamente porque tenía un acuerdo tenía la certeza de que iba a poder cubrir esos plazos no a través de una negociación político presupuestaria con eh bildu sino porque lo tenían atado en otro sitio entonces yo creo que la reflexión la tienen que hacer ustedes nosotros estamos dispuestos a hablar de cosas dispuestos a dialogar dispuestos a llegar a veces a acuerdos y otras veces no porque tenemos nuestra propia identidad política y nuestra base social nos pide que defendamos los intereses con los que nos hemos comprometido

a veces será posible y otras veces no será posible pero por nuestra parte

pues bueno pacten con el primero que pase pero si tienen claro que podemos coincidir en algunos acuerdos pues entonces búsquenos y nos tendrán pero eso sí no esperen que les regalemos las cosas

no digan que no salimos de nuestra zona de confort o que tenemos billete de vuelta cuando ustedes se han quedado como decía antes

señor casanova podemos endeudarnos más yo le he dicho antes que nosotros queremos estar en el euro queremos estar en la unión europea exige cumplir unos requisitos de déficit por lo tanto

y si no diga que no quiere estar no diga que queremos estar pero no cumplirlos porque no es posible

estamos a favor queremos cumplir incluso que se pongan más en europa

hay que hacer una reforma fiscal para recaudar más yo la única reforma fiscal que conozco que recaudó más fue la que bajó los impuestos en la época de aznar sí sí y la reforma fiscal

que se hizo aquí hace tres años las recaudaciones

cero se subió los impuestos para recaudar cero por qué no se aplican

luego podemos nos hablará de la recaudación del impuesto de sociedades en gran bretaña han bajado el impuesto de sociedades nosotros tenemos casi el más alto de europa

más que antes si nosotros somos partidarios de una reforma fiscal pero lo he dicho antes pero que beneficie a los ciudadanos y que consiga recaudar más porque las bases se amplían y porque hay más gente trabajando y por cierto se me ha olvidado decirle antes

y todos los ultras de izquierdas y de derechas de europa han coincidido ustedes la legislatura pasada en todo el mensaje antieuropeo y desde luego no somos nosotros los que
le felicitamos a donald trump eskerrik asko

sí gracias presidenta vamos a ver señor casanova

además de faltar al adversario político menospreciar el papel que ha tenido el partido socialista tanto en la conformación del gobierno

una participación escasa usted sabe que no es cierto o sea que en fin es su problema vamos a ver el problema de bildu es que no ha planteado absolutamente nada nuevo bajo el sol el problema de bildu es que ha salido de la negociación o le han echado de la negociación o le han

precisamente esta bancada sino algún que otro colectivo que forma parte de esa mayoría social de la que usted tanto se vanagloria

es el problema porque no queremos llamar a las cosas por su nombre y décimos que unos no han participado en la negociación cuando otros han tenido que salir obligados obligados vamos a ver los socialistas no han vetado en la negociación a ningún grupo político

a negociar y acordar estos presupuestos yo estoy convencida de que la euskadi libre e independiente

absolutamente de nada si fuéramos libres e independientes tenemos la reforma fiscal competencias fiscales propias y sin embargo ustedes

por recaudar más por tener más ingresos qué pasaría con el límite de endeudamiento pues lo mismo o asegura algo que vayamos a repartir de manera más justa a las diputaciones y a los ayuntamientos ese límite de déficit pues no

bildu ha pasado más tiempo intentando buscar una excusa para salirse de la negociación

y han tenido que ser otros los que le marquen esa posición o que les desmarquen de la negociación y no alcanzamos a entender por qué cuando hay mayorías o se pueden producir acuerdos bildu se va al rincón es que siempre desaparecen del plano

y así podemos estar en la oposición cómodamente ubicados sin tener que mirar como decía usted de reojo a elkarrekin podemos porque

hay respuestas para todo hay respuesta para la reforma fiscal porque sabe que se está haciendo una reflexión hay respuesta para los mil doscientos empleos más en educación y sanidad

que tenían previstos para la anterior legislatura plan de choque parados larga duración se lo he comentado con el programa marco

lucha contra la precariedad laboral pues lo mismo desprotección de miles de trabajadores oiga dígale a ese sindicato que les ha sacado de la negociación que se siente en la mesa de diálogo social

no exista esa desprotección y que se negocien los convenios como tienen que ser negociados no vemos en bildu ninguna propuesta alternativa que dicen tener y sin embargo nos dicen que

actitud no mano tendida actitud de verdad actitud realista demuéstrenlo yo creo que son capaces

no tienen ganas de acordar y sobre todo tienen mucho miedo a acordar ustedes saben por qué

bildu renunció en el pasado a formar parte de todo aquello que ha hecho avanzar euskadi porque renunció a participar en el diseño de la sanidad en el diseño de la educación pública vasca

con todas las mejoras que hacen falta los socialistas esos que según usted participan poco

en todo aquello y que estaremos en las reformas que vengan porque bildu además ahora tiene una oportunidad para hacerlo y pasará este debate a pesar del discurso del portazo señor casanova que usted ha hecho pasará el debate y cuando termine la tramitación presupuestaria

si algunos que se quedan con las luces de posición solo para que les vean

para ver lo que le hace falta de verdad a euskadi en las próximas décadas tenemos muchos retos ustedes fueron los que no invitaron al partido socialista a negociar ningún acuerdo de gobierno

a los socialistas no usted mismo muchas gracias eskerrik asko corcuera

bertsioa hau dela eta ez beste batzuk eman dutena aizu el pnv ortuzar creyó a partir del acuerdo presupuestario en álava que podría convencer a eh bildu y nosotros nos movimos

egun on denoi se ha hablado antes de tópicos en uno de los discursos

no es un tópico irrelevante aquel que dice que un gobierno muestra su verdadero rostro cuando presenta presupuestos podemos debatir muchas cosas en esta cámara

y estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas materias pero estos presupuestos son el eje de los debates más importantes que vamos a tener durante el año dos mil diecisiete son el lugar donde se decide qué es prioritario y qué no para el gobierno vasco con todo lo que supone para la ciudadanía vasca en su conjunto estos

porque aquí decidimos las cosas que afectan más directamente a su futuro inmediato una muestra

es la huelga de hambre que los colectivos sociales que se está desarrollando desde el pasado veinticuatro de marzo y con la que nuevamente hoy nos solidarizamos también desde este parlamento

inguruan no hay buenos presupuestos si no se gasta bien pero tampoco los hay si recaudamos mal estos presupuestos incurren en ambos errores simplemente son el pilar de un proyecto político que no tiene en consideración

ni las demandas más relevantes de la ciudadanía son los presupuestos de un gobierno sin un proyecto de país con más oportunidades y menos desigualdad más oportunidades y menos desigualdad la conclusión que sacamos

ha realizado un proyecto de presupuestos que se olvida o deja en segundo plano las principales preocupaciones de la sociedad vasca el empleo y la precariedad laboral la desigualdad económica la insuficiencia de recursos sociales o el creciente deterioro de pilares tan importantes como la educación y la sanidad pública

en la recaudación se trata de un proyecto que se basa además en un mayor endeudamiento y no en la búsqueda de recursos de quienes más pueden aportar y no lo hacen

que los impuestos directos tengan un menor peso en el total de las aportaciones significa que el gravamen a la mayoría social es superior y voy primero con esta cuestión al mismo tiempo que los impuestos directos pesan cada vez menos

bonificaciones desgravaciones o exenciones mediante las cuales se prevé que las haciendas forales dejen de recaudar más de seis mil millónes de euros en dos mil diecisiete de quienes más tienen y de quienes más ganan

una forma grosera de que quienes más tienen eviten pagar lo que realmente deben lo que realmente deben para que podamos ingresar más y para que podamos desarrollar nuestro país la variación de los ingresos que recibe el gobierno vasco a través de las aportaciones de las diputaciones es casi nula

que junto a la previsión de crecimiento del pib las aportaciones de las diputaciones forales

mientras los ingresos recibidos a través del endeudamiento ascienden en un once coma cuatro por ciento respecto a dos mil dieciséis el inmovilismo del gobierno

no es una propuesta cualquiera no hay más que ver el incremento de la desigualdad y de la precariedad laboral sobre todo si lo comparamos con el estado

no acometer esta reforma solamente se entiende en clave de seguir beneficiando a las élites económicas y a quienes ya tienen más es decir en contra de las mayorías sociales

a lo que en madrid le llaman agenda vasca que consiste por cierto en un ejercicio de imaginación sin precedentes que es apoyar los presupuestos del partido popular allí y a lo que

que es como se dice presupuestos a medida del partido popular en inglés más o menos lo que hemos entendido estas semanas tengo mis dudas francamente

eso de que esto solo va a durar un año como he leído hace poco lo mismo hay mala suerte y se alarga la cosa ya veremos voy a poner un ejemplo de en qué consistiría lo que proponemos y el motivo por el cual no hemos podido hablar en serio de

tengamos lo que tengamos tengan año tras año mayor protagonismo

que los impuestos directos los que gravan inmediatamente la capacidad económica tengan un menor peso en el total de las aportaciones

es mucho más pesada claro ejemplo de ello es el impuesto de sociedades las aportaciones realizadas por el impuesto de sociedades

en el dos mil quince al siete coma siete del total en dos mil dieciséis

qué sucede aquí básicamente euskadi necesita acometer una reforma fiscal

para poder mantener la estabilidad presupuestaria sin hipotecar a nuestra juventud euskadi debe acometer una reforma fiscal progresiva donde aquellas personas que más tengan paguen más en realidad es sencillo y está inventado en países de nuestro entorno europeo que es el espejo donde debemos mirarnos

pero nunca nunca cuando toca aprobar presupuestos la realidad es que para este gobierno sustentado por el pnv y el pse exigir más compromiso con el país

supone una línea roja que impide llegar a ningún tipo de acuerdo presupuestario nos parece una paradoja no sabemos si vasca o simplemente de los tiempos que en un parlamento

nos encontremos con un borrador como este primero

por segundo al pp como ya ven en su aprobación obviamente era responsabilidad del principal partido del gobierno el poder hablar con todos los grupos y nos hemos encontrado con bueno una serie de reuniones que no han tenido ni mucha voluntad ni mucho resultado aunque también he de admitir que el tono ha sido muy cordial pero

y dónde gastamos en este sentido elkarrekin podemos ha presentado una alternativa basada en los siguientes pilares

generación de empleo y reparto del empleo existente lucha contra la precariedad laboral potenciación del sistema de cobertura social vivienda

cultura y sostenibilidad y desarrollo económico en realidad no creemos que exista otra alternativa y no por cerrazón sino por sentido de país por posibilidades parlamentarias y por los datos que podemos leer periódicamente en el sociómetro y otros estudios sociológicos y económicos en el año dos mil dieciséis

sin embargo en el proyecto que se ha remitido por parte del gobierno se propone invertir más en el pago de la deuda que

el nueve coma treinta y seis por ciento del gasto público para pagar la deuda y un nueve coma cuatro por ciento en prestaciones y ayudas sociales el gobierno

algunos casos no podemos aceptar que este gobierno no quiera equiparar la subida de la renta de garantía de ingresos a la subida del salario mínimo interprofesional

como en otras prestaciones y no lo aceptamos nosotras pero tampoco lo acepta la ciudadanía ya lo he dicho antes

no podemos aceptar un aumento claramente insuficiente de las aes además que además

ya que este amplia sustancialmente los conceptos subvencionables que se recogían hasta el momento sin ampliar en exceso el presupuesto existe una supuesta apuesta del gobierno por poner en marcha una estrategia contra la pobreza a través de la aprobación del plan de inclusión social

no existe presupuesto destinado a ello aunque siempre vamos a celebrar cada paso que se dé en la materia de igualdad de género por pequeño que sea nos preocupa y nos parece que merece una explicación en serio que las declaraciones

no se corresponda en absoluto con los recursos efectivamente asignadas para continuar avanzando hacia la igualdad

y también de la falta de perspectiva de género en todo el presupuesto incluso si concediéramos que los veintidós millónes de euros a los que va a destinar es lo que se va a destinar a igualdad como dice el gobierno pero que están distribuidos en diferentes departamentos

sin poner recursos en medidas de fondo necesitamos más para avanzar hacia una sociedad más justa

y hablemos ahora de la principal preocupación de la ciudadanía vasca y la supuesta prioridad de este gobierno que es el empleo los planes de empleo presupuestados

ni suficientes falta mucho trabajo a realizar a la hora de perfilar estos planes que para nada están dotados de una cuantía suficiente como para que el empleo merezca el nombre

de empleo dentro de los doscientos nueve millónes de euros presupuestados para el departamento se esconden unos paupérrimos veintisiete millónes de euros destinados al trabajo

más concretamente en el ámbito de la inspección de trabajo y de seguridad social hay que señalar que la actual plantilla de personas inspectoras no se puede afrontar con un mínimo de eficacia

cotizaciones y condiciones de empleo en empresas esto es los delitos contra los derechos de las personas trabajadoras en cuanto a las políticas concretas

no puede ser que las horas extras ilegales sigan a la orden del día cuando hay muchas personas sin trabajo

se echan sustancialmente de menos medidas como las cláusulas sociales en los contratos públicos

las ayudas condicionadas a empresas o el control estricto

es una muy buena herramienta para la creación de empleo de calidad y desde el gobierno vasco se tiene la capacidad para ahondar en la creación de empleo público

en manera especial en los sectores más necesitados para la ciudadanía sanidad educación o servicios sociales y además con calidad

a estos servicios públicos y a la obligación de todo gobierno de mantener su accesibilidad y su calidad es aquí

que estos presupuestos estaban destinados a ser votados con el partido popular en general vemos con preocupación las políticas que ha ejecutado el gobierno vasco durante la última legislatura

servicios públicos cada vez más deteriorados y más precarizados estos presupuestos dejan claro que el gobierno vasco no apuesta seriamente por los y las trabajadoras del servicio público vasco

donde hoy en día uno de cada tres está en situación de interinidad

la precariedad alcanza el treinta y cuatro coma ocho por ciento en educación el treinta y ocho por ciento en limpieza y cocina sesenta por ciento

y estos presupuestos no están dirigidos a afrontar ese problema no entendemos sin embargo cómo sin hacer una apuesta por el empleo público de calidad el número de altos cargos aumenta en diecisiete miembros con un incremento de la partida de un doce coma dos por ciento mientras que la plantilla de asesores también aumenta en un veintiocho por ciento el presupuesto asignado a salud

mayor respecto al del año anterior lo cual por cierto celebramos pero con los presupuestos pasa lo que decíamos antes importa mucho dónde gastamos de manera sostenida

del entorno de los quince es como se ejecutan estos gastos esto significa algo muy sencillo no se hace el esfuerzo suficiente para avanzar hacia un sistema vasco de salud más social un sistema vasco de salud con mayor financiación y con un menor grado de externalizaciones y privatizaciones un sistema vasco de salud con una atención primaria

con una salud pública que sea la verdadera rectora del sistema en materia de educación más de lo mismo

y los numerosos problemas de infraestructuras de muchos de los centros educativos de toda euskadi los centros educativos

pero los presupuestos muestran claramente que el departamento de educación

y no de manera complementaria en su conjunto el sistema educativo vasco aumenta un cuatro por ciento los conciertos educativos siendo totalmente concertados los centros de educación especial proyectos de refuerzo educativo específicos y diversidad curricular tanto de infantil primaria

por el que se aprueba el reglamento de conciertos educativos establece que partiendo de la existencia

de la red privada y de la red de ikastolas la reordenación del sistema educativo vasco no universitario tiene como objetivo alcanzar la consolidación de una única escuela pública vasca democrática plural de calidad complementada con una única red privada de centros docentes sostenida con fondos públicos mediante un régimen de conciertos es

complementada y no por igual los presupuestos de dos mil diecisiete son un claro reflejo de cómo la red de centros educativos concertados no complementa la red pública

en este sentido apoyaremos presupuestos que refuercen la red pública y eviten que la red pública

de la red concertada también llama la atención que los presupuestos de dos mil diecisiete se recorte en la dotación económica

en el servicio de comedores baja un trece coma nueve por ciento en transporte escolar y acompañantes baja un tres coma cinco por ciento en limpieza de centros baja un siete coma cuatro por ciento

qué entiende el gobierno por un servicio público de calidad

ponérselo fácil al mismo partido popular que parece que van a apoyar en otros lugares vistas algunas de esas decisiones presupuestarias en realidad no hacía falta tanto esfuerzo

sin duda la educación vasca necesita más recursos incrementar los recursos destinados a educación dando prioridad de gastos a centros en medios desfavorecidos a satisfacer demandas de instalaciones de la red pública y ampliar la oferta pública

queda mucho trabajo por delante para revertir esta situación de obsolescencia en la que nos encontramos en euskadi no solo cambios en la financiación

no solo en qué invertimos y cuánto sino también como lo invertimos en la misma línea y avanzando en otras partidas nos encontramos ante un modelo de gestión cultural

creemos que la política cultural y lingüística que necesita euskadi debe hacer lo necesario para que la participación sea el eje de la misma empezando por los propios presupuestos

injusto e incapaz de dar respuesta a las demandas del sector y de la ciudadanía no existen políticas activas de empleo ni de igualdad

cuando es de sobra conocida la precariedad en la que se encuentran los y las trabajadoras

especialmente preocupante es el caso de las mujeres que además

ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones culturales más importantes observamos como los recortes de los años anteriores incumplimientos de compromisos se suma la falta de apuesta por el tejido cultural en euskadi y opinamos que son tanto territorialmente como estructuralmente desequilibrados

araba vuelve a encontrarse una vez más en una situación perjudicada pese a dar muestras de representar un sector fuerte y muy organizado

el cincuenta y dos por ciento del presupuesto se dedica a financiar euskal irrati telebista cuya emisión cultural desgraciadamente es altamente cuestionable hoy en día la partida destinada a la promoción del euskera crece poco mas de quinientos mil de euros

suena a marketing presupuestario la promoción del euskera sigue en caída libre y solo supone un cero coma catorce por ciento del peso relativo del presupuesto sobre el producto interior bruto

por parte del mundo euskaltzale ya por terminar a este debate no llegamos solamente con una mirada crítica y exigente y con afán de poner encima de la mesa las cosas que creemos que hacen falta para evitar la paradoja que mencionaba la principio de que el partido popular vaya a ser la bisagra

donde las fuerzas progresistas sin embargo suman treinta y ocho escaños llegamos también con la certificación de que era posible de otra manera por eso

a la mayoría de los departamentos y a buena parte de los organismos autónomos entes y sociedad públicas el resultado que no

y que por extensión la ciudadanía vasca no va a tener hoy es el siguiente un presupuesto más social en el que se incrementaría en un siete por ciento las partidas de educación siete millónes más en becas no universitarias un cuatrocientos veinticinco por ciento más las partidas para igualdad

un once por ciento la renta de garantía de ingresos con treinta y siete millónes más un dieciocho por ciento otras partidas relacionadas con políticas sociales un presupuesto más equitativo

del sector público al ámbito privado otros quince millónes un presupuesto más racional porque habríamos recuperado casi treinta millónes revisando aquellas partidas de gasto

las dietas la propaganda la publicidad innecesaria o la seguridad privada también recortando tres coma cinco millónes las partidas de sueldo a los altos cargos introduciendo a cambio dos millónes para aumentar laboral o funcionario como por ejemplo en la inspección de trabajo

un presupuesto más sensible a las demandas de la ciudadanía que pospondría inversiones que no tienen el apoyo de la ciudadanía

las prospecciones de gas en vitoria la pasante de donostia o el tranvía de leioa y por último también en lo que respecta al tren de alta velocidad nosotros planteamos posponer paralizar el pago de ciento treinta y cinco millónes en sobrecostes asociados a los tramos de construcción y posponer los tramos aún no iniciados

y la rentabilidad social del proyecto hacer las cosas mejor en definitiva

sí era posible aprobar un presupuesto más social sin superar los límites de gasto y sin necesidad de endeudar al gobierno vasco

señoras y señores del gobierno escuchando a la ciudadanía y poniendo sus necesidades en el centro de su quehacer y también era posible un pacto por una reforma de la fiscalidad dirigida a que paguen más quienes más tienen que habría permitido aumentar de forma sustancial las partidas de gasto social

habría permitido crear más empleo y de más calidad eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

me toca a mí resumiendo

para nuestro grupo parlamentario unos presupuestos públicos sí deberían ser una herramienta de distribución de la riqueza del país y por eso décimos y ha explicado muy bien mi compañero lander que deben empezar por los ingresos

basada en esa frase que ya se ha dicho quien más tiene que más pague y la realidad

más allá de lo que diga la constitución es que quienes principalmente sostenemos las arcas públicas somos las y los trabajadores

de sociedades efectivamente como se ha dicho antes me voy a referir a él el impuesto de sociedades en la realidad apenas llega al doce por ciento o como muy bien reconoció la señora tapia el otro día en muchos casos ni siquiera llega

y para nosotros hace falta una fiscalidad justa para poder tener unos presupuestos justos y por eso creemos que como lo primero no pasa

unos presupuestos justos tenemos al contrario unos presupuestos continuistas y conservadores que desde luego no van a molestar a las élites

y no van a dar respuesta sobre todo y esto es lo más grave a quien más los necesitan a las personas que peor lo están pasando

o que tienen que recurrir a prestaciones y ayudas públicas para sobrevivir y para vivir justo a esas a las que más se necesita este presupuesto lo que trae

y trabas para acceder a esa cobertura pública que tanto necesitan solo por esta razón ya mi grupo debería oponerse a estos presupuestos

a eso que suelen llamar clase media trabajadores asalariados autónomos pequeños empresarios no van a dar respuesta con las mismas políticas de presupuesto

al desempleo a la precariedad al empobrecimiento general y a la falta de perspectiva de vida

mayor por lo tanto nosotros creemos que son unos malos presupuestos en ese sentido

porque el gobierno no tenía mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlos en solitario y por lo tanto necesitaba al menos la abstención de uno de los grupos de la oposición si miramos a la cámara en este parlamento hay tres

por un lado hay dos coaliciones de izquierda progresistas y por el otro lado hay un partido de derechas nacionalista en este caso nacionalista español por lo tanto el gobierno tenía diferentes sitios a donde mirar a la hora de negociar sus presupuestos podría haber mirado a la izquierda del país rica y plural

a la derecha del partido popular a la derecha de mariano rajoy y de maría dolores de cospedal desde el minuto cero y a pesar de que nuestro grupo se ofreció a negociar los presupuestos diferentes miembros del gobierno salieron a decir que elkarrekin podemos se autoexcluía de las negociaciones cuando no era cierto había una intención deliberada en colocar en la opinión pública el mensaje de que elkarrekin podemos no quería negociar los presupuestos y eso no es verdad otra cosa diferente

y lo reconocimos desde el principio estábamos siendo exigentes sí queríamos ser exigentes porque entendíamos que quienes nos han votado nos pedían ser exigentes

nos pedían ser exigentes en cuanto a la defensa de los más vulnerables y por eso queríamos hablar de la rgi y nos pedían ser exigentes

no solo de desempleo sino también de las condiciones en el empleo no obstante

el gobierno en nuestra opinión tenía decidido desde el principio con quién prefería negociar

nosotros creemos que esto era así por dos razones fundamentales en primer lugar

iba a ser menos exigente que los grupos de la izquierda porque el partido popular lo que quería fundamentalmente obtener de esta negociación es allanar el camino para conseguir posteriormente el posible apoyo del pnv a la aprobación de los presupuestos generales del estado y en segundo lugar porque en nuestra opinión

las políticas sobre todo económicas del partido popular y del partido nacionalista vasco no están tan alejadas

y el gobierno del estado efectivamente defienden los mismos intereses los de las élites los de la oligarquía los de la gran burguesía por eso

que los presupuestos que se traen aquí no son los presupuestos que interesan a la mayoría social del país y hemos corroborado que no es una consideración solo nuestra sino que además lo han dicho así todos los sindicatos digo todos los sindicatos y numerosísimos agentes sociales

también porque detrás de los números detrás de los presupuestos hay ideología y nosotros pensamos creemos que detrás de estos presupuestos y creo que señor damborenea me ha dado la razón cuando antes ha explicado

que detrás de estos presupuestos está la ideología neoliberal que en este caso trae a esta cámara la nueva troika a la que ya me referí en otra ocasión

y el partido popular nosotros nos oponemos a estos presupuestos pensamos que se podían haber hecho

hubiera preferido mirar a la izquierda de la cámara y no haber mirado al partido popular

yo sí que voy a decir que a mí personalmente sí que me influyen las posiciones de los sindicatos entre otras cosas porque la representación de los delegados sindicales

legalmente tan legítima como la que tenemos quienes hemos sido elegidos para esta cámara en las elecciones políticas y ellos defienden a los trabajadores son elegidos por las y los trabajadores

desde luego que a mí sí me van a influir como decía mi compañero lander nos oponemos a estos presupuestos y hemos perdido la oportunidad
de unos presupuestos mejores para la mayoría de la gente eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

muchas gracias señora presidenta yo no sé por qué el término neoliberal a mí me puede llamar liberal directamente lo del neo no termino de entenderlo

algo que puedo entender que desde los grupos de la oposición que no han pactado

exigentes con el gobierno para llegar a un acuerdo que nosotros que por lo visto éramos unos fletes que pasábamos por allí y como en madrid necesitamos que nos voten

a cambio de nada que bildu o podemos

ahora que en la última intervención del portavoz del partido nacionalista vasco en su debate con bildu por ver quién es más nacionalista y estas cosas

a mí me da qué pensar primero si se ha leído el acuerdo que hemos firmado

y que evidentemente va más allá de estos presupuestos esto que hemos firmado porque digo yo que este acuerdo que hemos firmado es para cumplirlo

hablamos del diecisiete al veinte y es para cumplirlo y que cuando hablamos de plan de apoyo a las

es para cumplirlo y que cuando hablamos de inversiones públicas y cómo se tienen que ejecutar es para cumplirlo

y cuando hablamos de materia de apoyo a las familias y la conciliación de la vida laboral y familiar y va durante toda la legislatura en los cuatro años

y cuando hablamos en materia de educación lo que décimos en este documento me planteo que es para cumplirlo y cuando hablamos de

y gestión adecuada planteo que es para cumplirlo y cuando en materia fiscal décimos que cualquier planteamiento de reforma fiscal deberá contemplar un amplio acuerdo que no traslade las rentas medias y bajas una merma de sus ingresos

y favorezca el ahorro y la inversión es para cumplirlo y es evidente

que este gobierno tenga presupuestos y nosotros planteamos que la estabilidad es muy importante para que la economía vaya bien

tampoco se podría contar con los ciento cincuenta millónes de euros que se incrementa a este presupuesto porque no tendría este gobierno la capacidad de poder

ni por nueve ni diecinueve ni veintinueve ni treinta y nueve ni cuarenta y nueve millónes de euros ha sido por esto que tenemos aquí firmado y esto es para nosotros lo que es importante y a esto me he referido yo con el modelo social yo no sé si

le parece muy relevante o no o si se lo ha leído o no pero es evidente

pues esto no ha sido así y esto está reflejado en este documento

que se nos aclare si esto va a quedar en papel mojado antes de empezar a estrenarse porque claro tendríamos que saberlo nada más y muchas gracias

presidenta los socialistas vascos no compartimos ninguno de los argumentos en los que fundamenta elkarrekin podemos su enmienda a la totalidad

rechazamos esta enmienda porque nosotros sí creemos que este proyecto aunque mejorable sin duda entendemos que es un proyecto válido adecuado y el necesario para hacer frente a los problemas y necesidades de la ciudadanía

padeciendo muchos problemas a diario porque se basa en un diagnóstico que sí se ha ajusta a la realidad vasca y para nada olvida las preocupaciones de la sociedad sobre la precariedad laboral o la desigualdad económica es más este presupuesto propone cantidades económicas que harán posible el programa de gobierno acordado entre el partido nacionalista vasco

cuyos objetivos principales son la recuperación económica la creación de empleo el mantenimiento de políticas públicas de sanidad educación y las políticas sociales

lo que nos propone la enmienda a la totalidad de podemos es que hagamos tabla rasa que empecemos de nuevo como si nada de lo hecho hasta ahora hasta que han llegado ellos hubiera sido de utilizad para euskadi nos plantean como ese chiste de mafalda que que me bajo porque devolver los presupuestos sería mantener la prórroga presupuestaria

sería decir no al incremento salarial del uno por ciento de los empleados públicos sería decir no a las ope en varios servicios públicos sería decir no

sería impedir que se ponga en marcha el programa marco de empleo

sería impedir que se aumentasen las medidas y el apoyo al empleo juvenil

sería impedir que hubiese medidas para reactivar económicamente las zonas industriales más desfavorecidas por la crisis sería decir no a las partidas de refuerzo para impedir

sería decir no a dedicar el ochenta por ciento de las viviendas públicas al alquiler

habría que decir no si hacemos caso a su enmienda a la totalidad

hacer de la reforma fiscal la piedra angular del debate presupuestario y político a pesar de que tienen abierto el registro para sus propuestas en esta cámara desde el mes de octubre

a traer esto tan urgente de los recargos fiscales y cuando se decidieron a traerlo y a registrarlo en el registro de la cámara lo trajeron una semana después de que el gobierno les presentara un proyecto de ingresos y gastos y por qué trajeron por la vía de urgencia ese tema porque ustedes sí tenían urgencia en armarse un traje frente al proyecto de ingresos y gastos

el gobierno vasco y en ese traje a medida con el que se pretenden armar incluyen otra piedra angular en el capítulo de gastos la renta de garantía de ingresos y ustedes piden aquí en euskadi lo que no hacen allí donde gobiernan y les voy a poner el caso

allí decidieron restringir el acceso a la renta básica a unas cuantas personas decidieron condicionar el acceso a otras y ligaron expresamente la actualización de la renta al índice de precios al consumo y defendiendo esto en navarra allí no hablan de rentas básicas de vergüenza aunque sean inferiores a las rentas vascas

derechos que pretendemos ampliar con la protección social a otros colectivos que no contempla la ley actual con el proyecto de presupuestos y desde el rigor y la responsabilidad la sociedad vasca debe saber que cuenta con un sistema de protección social que protege a las personas

elkarrekin podemos se contradice al enfatizar negativamente su discurso a la vasca sobre la renta de garantía de ingresos

que su formación que podemos pone de ejemplo para todo el resto de españa y espero que llegue el día en el que ustedes señoras y señores de elkarrekin podemos

un nuevo pacto social que garantice el sistema vasco de protección social que incluyan nuevas situaciones no contempladas en la actual ley en vigor ustedes con su voto avalaron que en mayo de este año tengamos el informe sobre el que perfeccionar el actual modelo de protección social

expreso por parte también de los socialistas vascos ustedes marcan hoy con esta enmienda a la totalidad en su discurso las distancias con aquel pacto

en que el eje del debate es lo que aún no hemos conseguido con el mejor modelo de protección social que hay en españa y es que cada vez

para ayudas sociales sea menor porque habrá disminuido la cronificación en las ayudas sociales de las personas y gentes que conforman la ciudadanía vasca por eso les invitamos a sumarse

nuestro modelo de protección construido en los últimos treinta años tiene margen para mejorar sin duda pero este modelo de protección es de lo mejor que hemos sabido hacer juntos en nuestra historia y es una de las razones por la que tiene sentido el autogobierno un autogobierno que para resolver los problemas de la ciudadanía en este caso

más vulnerables y que peor lo pueden estar pasando tiene un sistema amplio de cobertura

ejemplo en toda españa y esperamos que quienes hoy se oponen vayan situándose en la escena política vasca y puedan implicarse en participar en la construcción social de euskadi en la que otros llevamos desde siempre es muy posible que en el futuro seguramente hablaremos

de algunas de las cuestiones que hoy nos han traído aquí a esta sesión porque en esta cámara se habrá avalado ya la ruta de algunas de las reformas que queremos abordar porque

la reforma del pacto educativo el desarrollo del decreto del derecho subjetivo a la vivienda el programa marco de empleo y reactivación social queda mucho camino por andar todavía pero ni los casi doscientos sesenta y siete millónes de euros que ustedes plantean como elkarrekin podemos para modificar el presupuesto son razones para una enmienda a la totalidad

no es un cambio de modelo social para euskadi y nosotros los socialistas tenemos dos premisas cada vez que hemos estado hablando y negociando un presupuesto primero que ni un solo paso atrás en los derechos conquistados por la ciudadanía vasca ni un solo paso atrás y también siempre hemos promovido

en los que no se da un solo paso atrás en los derechos conquistados

de la resignación por mucho que a algunos les duela hoy toca afrontar debates sobre reformas estratégicas que están apuntadas en el programa de gobierno de esa euskadi para dos mil veinte y yo espero que elkarrekin podemos desde el principio de realidad

para influir en unos acuerdos que serán de país y de relevancia para el devenir

por tanto yo lamento que hayan presentado ustedes esta enmienda a la totalidad pero también me queda muy claro que ustedes no tenían ninguna intención

de gobierno y por lo tanto no tendrán seguramente por las derivaciones que ustedes han comentado en diferentes ruedas de prensa no tenían ninguna intención de negociar unos presupuestos que para ustedes no les parecen justos y al gobierno le parece que son unos presupuestos y que de verdad dan respuesta a las necesidades de las personas que peor lo están pasando no son unos presupuestos de recortes ni unos presupuestos que planteen trabas

y dan respuesta a toda la ciudadanía vasca que lleva mucho tiempo esperando que y en la política nos pongamos de acuerdo

todos solamente espero que elkarrekin podemos tenga en un futuro no muy lejano la oportunidad de hacerlo nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

hori da egin duzuena es una propuesta que es incoherente incongruente no tiene homogeneidad

las prioridades a las que vuestra enmienda de totalidad responde ulertzen dut

aurrekontu batean ustedes plantean enmiendas parciales por un importe gastos que incrementan por ochenta y tres millónes

millónes me quieren ustedes decir con una variación de menos de un uno por ciento del presupuesto dónde

ese cambio de modelo ese cambio de modelo cómo pueden plantear ustedes ustedes no sabían qué hacer con este presupuesto ustedes cogen el presupuesto de gastos y de los ochenta y tres millónes que plantean en los gastos prácticamente el cincuenta por ciento es la rgi

añadido al uno coma cinco por ciento que ya va incorporado en el proyecto de presupuestos una cantidad mayor mayor que la que van a tener muchos trabajadores en sus convenios

y muchas pensiones que van a estar por debajo de ese uno coma cinco por ciento y fuera de eso ustedes díganme todo ese discurso que hacen dónde alguien reflejado en las enmiendas parciales que ustedes plantean

buscan el titular se pierden en el titular pero no hay más

una enmienda a la totalidad y un conjunto de enmiendas parciales que cambiaran radicalmente el planteamiento ustedes están hablando por la vía de ingresos del endeudamiento si quieren podemos mirar cuáles son los endeudamientos de otros sitios y ustedes están hablando de fiscalidad del que más paga

gana más pague y el que menos gana menos pague le voy a dar unos datos por ejemplo en irpf en euskadi los que menos ganan hasta doce mil euros de renta no pagan en ningún sitio

en euskadi es donde menos pagan hasta veinte mil euros en euskadi es donde menos pagan

en euskadi es el segundo sitio en la comunidad autónoma donde más

de gastos fiscales sabe de dónde proceden esos gastos fiscales pues un cincuenta y cuatro por ciento del impuesto sobre el valor añadido

y superreducidos nosotros no tenemos capacidad normativa en el impuesto sobre el valor añadido pero ustedes están allí donde sí hay capacidad normativa presenten iniciativas allí en madrid para cambiar para quitar esos tipos impositivos sí sí

podemos va a plantear en madrid en coherencia con lo que están planteando

ustedes están hablando de una maraña de gastos fiscales en el impuesto de la renta de personas físicas

el dieciocho por ciento sabe de dónde proceden pues de muchas deducciones

pensiones orfandad familias por tener hijos a su cargo por aportaciones a epsv también ustedes están en las juntas generales que tienen competencia presenten iniciativas para quitar esas deducciones

no hagan un discurso que es muy fácil hacer un discurso sin argumentos mientras no nos den argumentos reales nosotros tenemos serias dificultades para contraargumentar mientras ustedes no sean coherentes y allí donde estén hagan lo que dicen ustedes están engañando a la gente están engañando

este es absolutamente cierto es un ejercicio de irresponsabilidad política ustedes están hablando de desigualdades

de desigualdades sociales de que el sistema sanitario

escuchando las cifras que da el consejero obviamente hace falta estar loco o no conocer lo que es un sistema de salud

es una satisfacción para todos los vascos y las vascas oír estas cifras que nos da el consejero de salud le parece a usted autocomplacencia lo que digo verdad pero es una sí señor martínez pues las he interpretado porque no son mis palabras

del señor uria no son mías las he interpretado porque eso es lo que el señor uria dijo obviamente es una satisfacción oír estas cifras

para estar en desacuerdo es una satisfacción para todos los vascos y las vascas oír estas cifras no es mil seiscientos diecinueve permítame una tontería

quiero decir es la cifra que yo he dado a la federación ustedes

no hablen de fiscalidad no hablen de maraña de gastos fiscales sin proponer enmiendas no hablen de gastos cuando este es el discurso real que hacen y estoy segura

cuando fuera de aquí están con quienes son su compañeros de partido estoy segura que cuando hablen

lo alabarán y lo utilizarán como ejemplo estoy segura estoy segura porque si no les engañan también a ellas y a ellos estoy segura

estoy segura que en el ámbito educativo también por cierto señor martínez usted ha dado que los comedores transporte limpieza bajan porque las licitaciones han sido menores no porque el servicio sea menor no porque el servicio sea menor

sea buena de calidad y se mantenga que es lo que se hace planes de empleo desarrollo económico saben ustedes en el resumen de las enmiendas

de internacionalización en el departamento de desarrollo económico para destinarlo a cooperación que está muy bien destinarlo a cooperación pero lo que no puede pretender es decir que en el desarrollo económico y en la internalización lo que quieren es

el símbolo de la internalización de euskadi y con eso internacionalizamos las empresas y con eso potenciamos el desarrollo económico de euskadi

esta enmienda de totalidad y en el conjunto de enmiendas parciales que presentan dónde están porque son ochenta y tres millónes de euros

muchas de las propuestas que ustedes estaban planteando las podían haber aceptado las podían haber abonado con ese importe las podían haber abonado muchísimas

ustedes en desarrollo económico se cargan en parte en parte porque eso es lo que hacen en desarrollo económico su política económica y de reactivación económica se cargan en parte

cómo se gestiona esa cuenta incluyen una partida de cinco millónes para la fuente

les hubiera llegado plantean más dinero para alokabide y para vivienda por cierto

en doce coma nueve millónes de euros plantean una subida de tres millónes les hubiera llegado becas plantean ustedes siete millónes les hubiera llegado

para salud pública señor uria que es lo que usted pretende les hubiera llegado les hubiera llegado porque no plantean básicamente más diferencias

se cargan todo lo que hay de informática

fuera gratis incluyen una partida dicen quitar las licencias

fuera gratis pero ustedes creen que el gobierno vasco no utiliza el software libre

y cuál responde mejor ustedes se calzan por completo las seguridad privada de los locales

diciendo que lo haga la ertzaintza como segunda actividad de la ertzaintza pero luego en el capítulo primero lo dejan igual nos cargamos la seguridad privada pero no ponemos ni uno en capítulo primero qué se piensan que la ertzaintza está mirando las musarañas

se cargan todos los servicios exteriores de todos los sitios menos en igualdad en igualdad sí podemos llevar servicios exteriores

diciendo que son discrecionales pero luego resulta que incluyen ustedes subvenciones nominativas con qué criterio con qué criterio

el criterio de ezker batua son sumas de criterios el criterio de cada portavoz de uria de becerra

no tiene homogeneidad es un ejercicio de irresponsabilidad política lo que ustedes han hecho eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko

a nosotros en la réplicas o empezar por todo esto último

como pasa siempre cuando tenemos un debate de estos nos encontramos con medias verdades medidas verdades porque cuando hemos estado reunidos cuando hemos hecho esos planteamientos que tú nos has enlistado a nosotros ni siquiera se nos dirigió un documento en el que pudiéramos hablar de nada se nos llamó y se nos dijo oye mira esto de la rgi no y ya está

de cuestiones has citado también al señor uria que yo creo que está muy bien

el cómo alabó unos números que luego también hay que escuchar un poquito porque nosotros cuando hacemos una crítica

estamos haciendo la crítica porque creemos que se puede mejorar y porque creemos que se puede prioridad y porque

porque no os gusta esa crítica y el señor uria lo que hizo es primero dar una serie de números

y luego hacer una crítica a una cuestión muy concreta y esa crítica también hay que tomarla en cuenta pero luego también siguiendo si hablamos

ertzaintza y segunda actividad lo que sucede en la ertzaintza con la segunda actividad no es

es que en vez de crear plazas de segunda actividad lo que se hacen es adaptar las plazas de aquellas personas que podrían hacer segunda actividad

para que estén haciendo el mismo trabajo que hacían antes con unas incapacidades eso es lo que se hace y entonces siguen manteniendo un montón de contratos de seguridad privada que son una millónada

nos cargamos las licencias que son innecesarias y que se pueden cubrir con servicios de software libre

en ese mantenimiento y una oficina local que pueda permitir hacer ese trabajo de atención

es en esa oficina que puede permitir y nos olvidamos de empresas externas lo primero que lo que nos producen es un montón de gasto y cuando necesitamos productos concretos en vez de gastar en software privativo lo que hacemos es fomentar la economía local

internacionales en empresas locales que ganarían muchísimo más dinero si nosotros pudiéramos poner ofertas públicas para esos productos que creamos y un nuevo modelo económico respecto de la informática eso es lo que sucedería

y a lo sencillo y luego si vamos directamente a donde está este mismo debate también

aquí el problema de la rgi ya no es de la cantidad más o menos o de cuánto cobran los trabajadores o no el problema es de modelo el problema es de modelo porque vosotros queréis una rgi que sea menos que el salario mínimo interprofesional

que el umbral de la dignidad está en el salario mínimo interprofesional y como el umbral de la dignidad está en el salario mínimo interprofesional que

la rgi en proporción como dice la ley lo que tendría que estar es equiparada

eso es lo que sucede y al final nos encontramos como has dicho medias verdades y podríamos hablar también de las juntas generales de lo que supone

o cómo con créditos comprometidos tenéis secuestrados mucha parte de los presupuestos que podríamos desarrollar aquí

que tenemos aquí con los presupuestos que tenéis en las juntas generales efectivamente tiene que ver con el sistema democrático pero bueno

y tampoco quiero entrar más porque una vez más se ha demostrado que es una cuestión de modelo que no es una cuestión

las cuestiones porque donde nosotros interpretamos recortes ustedes no los interpretan

simplemente y ya está pero es que tampoco pasa nada porque tenemos dos modelos diferentes porque además y aquí voy a lo que ha pasado con el señor damborenea el señor egibar ha preferido asumir ese discurso

y les daba gratis el voto porque es un discurso que les viene muy bien para ocultar que su modelo económico y social

de lo que quieren decir a la ciudadanía eso es lo que pasa que es mucho más cercano y que les ha resultado mucho más fácil y ahí

y que les ha regalado gratis un voto no la realidad es que les ha resultado muchísimo más fácil negociar con el partido popular

y social que tienen con este partido es mucho más cercano de lo que quieren plantear con el partido

que es un partido de recortes de corrupción y de negación de derechos nacionales en euskadi

esa es la cuestión que el modelo social es mucho más cercano y que además hemos visto cómo se pretende ocultar esa cuestión

voy a aprovecharlo y voy a tomarlo porque me viene muy bien para que esa evidencia

de presupuestos que ni siquiera se ha negociado aquí

parte de la política que nosotros hemos criticado en los meses que llevamos aquí

nuestros presupuestos con nuestros derechos competenciales con lo que nos corresponde por ley como pueden ser

pero qué prefieren comprometer esos recursos prefieren comprometer esas competencias a negociaciones partidarias para aprobar unos presupuestos eso es lo que sucede y que siguen comprometiendo el futuro y desarrollo de este país a acuerdos con el partido popular

parlamentario que permitía un modelo de desarrollo social mucho más amplio y mucho más progresivo y habéis decidido pactar con los del modelo neoliberal por qué

y luego ya refiriendo al partido socialista

de que se cumple el pacto de gobierno en esto claro

es noventa y seis por ciento partido nacionalista vasco cuatro por ciento partido socialista pues evidentemente es fácil que se cumpla el pacto de gobierno sin que haya una influencia directa ni indirecta del partido socialista porque nos hemos encontrado con unos presupuestos que obviamente no tenían ninguna influencia de este partido

porque si en navarra hay que hacer mucho más esfuerzo todavía para implantar un modelo de desarrollo social

mucho tiempo para alcanzar el nivel que hay aquí es precisamente porque vosotros con vuestro partido en navarra habéis sostenido durante mucho tiempo

muchas veces podríais haber cambiado el gobierno que existía en navarra y qué es lo que pasa que como vuestro partido no os dejaba

ahora hay que ir mucho más despacio de lo que se va en euskadi para desarrollar un modelo social en navarra

cuando podríais haber estado dentro eso es lo que sucede porque darle además un sí a estos presupuestos aunque vosotros hayáis hecho una lista de sí a estos presupuesto es decir no a la ciudadanía

a un montón de gastos que no son prioritarios para la ciudadanía y decir no a un modelo social de desarrollo eso es

muchas gracias señora presidenta efectivamente hay dos modelos y su modelo de la rgi nosotros estamos completamente en desacuerdo yo le he entendido a usted perfectamente desde el principio nosotros no queremos un modelo en el que la gente pueda vivir sin trabajar porque nos apuntamos todos cuando antes hablábamos de liberales y de comunistas eso ya se inventó en su día

tenemos que tener un modelo como el que tenemos que garantice la dignidad de las personas

en casa que por ir a trabajar pues no tiene ningún sentido y eso es lo que ustedes han propuesto con sus enmiendas y por cierto

después de oírle no sé si los más reaccionarios somos nosotros o upn o le queda algún partido por ahí porque cada vez que cita dice que es más reaccionario yo le voy a decir que somos los más progresistas

y me va a entender somos los más progresistas porque nosotros garantizamos las pensiones somos los más progresistas porque garantizamos que se pueda cubrir y pagar la rgi y somos los más progresistas

sostenible porque si no es sostenible se cae y ustedes plantean que sea insostenible quedando muy bien en un discurso buenista

nosotros somos la garantía de que exista ese progreso y que ese progreso se mantenga incluso en épocas de crisis económica

porque hemos destinado en el acuerdo más dinero a la cooperación internacional de la que ustedes planteaban en sus enmiendas eskerrik asko damborenea jauna

presidenta vamos a ver esto de menospreciar al adversario diciendo que solamente forma parte del cuatro por ciento del presupuesto y por lo tanto actúa en el programa de gobierno con el cuatro por ciento

pero mire para los socialistas señor martínez la política

para mejorarla nosotros pusimos los escaños y los votos que consiguió el partido socialista en las autonómicas del año pasado para influir de verdad en las decisiones que pudiera tener este gobierno formamos parte del gobierno para influir

del gobierno en la toma de decisiones que van a afectar a toda la ciudadanía nosotros no hemos venido a este gobierno para entender la política como un reparto ni de sillones ni de dinero ni del cuatro por ciento somos corresponsables del cien por ciento de este presupuesto para que le quede claro igual es como no estuvo en la comisión no se enteró vamos a ver a usted le molesta mucho esto de navarra oiga pero si forman parte del gobierno del cambio

ya están en el gobierno del cambio aceleren aceleren

ahí va no podemos correr tanto ahí va es que entonces las cosas no son tan justas como pensábamos han corrido para poner el ipc

para eso han corrido para eso han corrido en aquella ley de otoño y hay cuestiones en el argumentario de elkarrekin podemos que a mí me preocupan sinceramente la principal de todas es que ustedes erre que erre con negar la realidad

como si fuera la primera vez en los treinta y siete años que va a tener mañana cumple esta cámara treinta y siete años que alguien llega aquí a preocuparse por las gentes de los pueblos y ciudades según dicen ustedes en su enmienda a la totalidad como si en los pueblos y ciudades de euskadi durante treinta y siete años no hubiese habido ni centro de salud

por eso le he dicho en mi anterior intervención la enmienda a la totalidad de bildu

es una enmienda a las casi cuatro décadas del autogobierno en euskadi porque hemos conseguido construir una comunidad mejorable con defectos por supuesto claro que sí pero hemos conseguido construirla no partimos de la nada

tabla rasa es que nada ha existido hasta que han llegado ustedes nada ha existido hasta que han llegado ustedes hasta niegan que haya un compromiso para la revisión de la fiscalidad si son ustedes lo saben perfectamente que tenemos los socialistas adquiridos y el gobierno un compromiso de la revisión de la fiscalidad que por cierto fuimos los socialistas en el año dos mil trece quienes provocamos aquella reforma fiscal fuimos los socialistas quienes provocamos la reforma fiscal

que dedicar gasto a políticas sociales y de empleo oiga y por qué no hablan

porque es la misma cantidad por qué no hablan de cómo se va a dedicar en sanidad casi se triplica el gasto de la deuda por qué en el programa marco de empleo y reactivación económica el gasto va a ser casi

que ese cargo de la deuda porque es que no entendemos a dónde quieren llegar

por la suma de ayudas que se dan y esto se parece mucho a esas políticas asistencialistas de los partidos a los que ustedes tanto critican

a todo el que lo necesite cómo no pero también somos partidarios de poner los medios para conseguir que cada vez esas ayudas las necesiten menos personas

a aquellas personas que requieren de las ayudas sociales nosotros los socialistas aspiramos a una sociedad en la que nadie

a buscar ayudas porque eso significará que hemos acertado en las políticas

porque habrá empleo digno que solventará los problemas de salarios y ustedes pasan soberanamente y pasan muy de lado del tema

muchos derechos sociales porque ustedes desde elkarrekin podemos
asko corcuera andrea sí ahora mismo acabo sí gracias presidenta nada treinta segundos

podemos piensan que estamos en euskadi jugando a ese juego de los sims no sé si lo conocen pero es un juego de simulación

ciudades pueblos organizaciones sociales y va poniendo una casita un ambulatorio y un hospital y los bomberos

están haciendo eso jugar con euskadi al juego de los sims solo que aquí llevamos ya

años casi de autogobierno no hemos nacido hoy hoy no parte euskadi de cero sino que aquí llevamos luchando por esas conquistas sociales desde hace muchísimo tiempo

en que no saben aceptar la realidad la niegan al mejor estilo de trump y con ello solamente buscan un momento de gloria y los socialistas estamos pensando en los que vengan detrás que sea mejor eso que venga detrás que lo que ya supimos construir

orain atera berri dago encuesta de pobreza y desigualdades sociales euskal gizartekoa eta dio entre dos mil catorce y dos mil dieciséis

se traduce en general en una nítida mejora de los indicadores de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar de mantenimiento ligados a la insuficiencia de ingresos eta hau guztion

aldekoa cuarenta y seis contra beraz lege proiektua

la celebración del treinta y uno de marzo como día internacional para la visibilidad nació en míchigan en el dos mil nueve a través de las redes sociales por iniciativa de la activista

visibilizase a las personas trans en contraposición al día de la memoria trans donde se recuerda a las personas asesinadas del colectivo en los últimos

de sus derechos en todo el mundo la existencia de personas trans no es un fenómeno de hoy han existido desde siempre en todas las culturas de la humanidad siendo muestra de la diversidad humana sin embargo esta realidad ha sido admitida

en algunas se ha aceptado en mayor o menor grado y se han articulado mecanismos sociales y leyes que promuevan la integración mientras en otras utilizando pseudoargumentos religiosos médicos y legales se ha considerado la diversidad de género desde un pecado a una enfermedad un delito justificando así graves violaciones de los derechos humanos eusko legebiltzarrak bat egiten du egun horren ospakizunean trans